euskadi no puede abstraerse del ámbito económico y social europeo las políticas públicas desarrolladas en europa son nuestro escenario de juego natural

con la orientación de las políticas económicas europeas por no tener en cuenta la componente social no valorar las consecuencias de las decisiones adoptadas la política de austeridad estricta y reajuste fiscal tuvo costes para la sociedad con ejemplos claros como grecia portugal e incluso españa hoy nos encontramos en un momento de cambio

gracias a la implicación del banco central europeo se han planteado medidas para la reactivación reducción del tipo de interés hasta el mínimo histórico

o la penalización del exceso de liquidez en los bancos estas medidas van en la buena dirección y deberían facilitar el acceso al crédito de las empresas y familias pero no son suficientes las medidas solo de carácter financiero

además de limitado puede tardar en sentirse he defendido ante las autoridades europeas el paso

austeridad a una política de estímulo a la economía productiva real medidas decididas y de envergadura orientadas a generar crecimiento

competitiva y cohesionada respondo a la primera cuestión de dónde venimos y qué hemos hecho el año pasado euskadi se encontraba en recesión el gobierno tuvo que gestionar unas cuentas prorrogadas muy ajustadas

y el gobierno dispone de seiscientos millónes menos de euros que hace dos años ante esta difícil situación qué hemos hecho tres medidas disciplina en la gestión garantía de los servicios esenciales y abrir un nuevo futuro económico para el crecimiento en primer lugar disciplina en la gestión hemos cumplido los parámetros de déficit que son obligatorios hemos negociado y aprobado una planificación con un horizonte de tres años con ello contenemos un endeudamiento cuya evolución podría haber tornado inviable

en enero la comisión mixta del concierto económico ratificó los acuerdos bilaterales alcanzados entre la administración vasca y del estado en materia de estabilidad presupuestaria esta misma comisión mixta ha acordado la modificación del concierto

nuestro autogobierno incorporando nuevos ingresos y concertando nuevas figuras tributarias son acuerdos con el gobierno español del partido popular

hoy la consolidación fiscal es un hecho y alcanzar el equilibrio presupuestario en términos estructurales es un objetivo necesario

limita nuestra capacidad de acción lo hemos asumido con total responsabilidad este año hemos debido destinar ochocientos millónes de euros al pago de intereses y amortización el próximo ejercicio serán

el diez por ciento del presupuesto del gobierno como referencia hace tan solo cinco años esta carga se encontraba en el entorno

de devolución de la deuda este próximo año el límite de déficit se reduce en tres décimas por lo que en igualdad de condiciones contaremos con otros doscientos millónes menos cuatrocientos millónes son en total cuatrocientos millónes menos lo que condiciona y limita nuestra disponibilidad a todo el gobierno le gustaría

disponer de más recursos pero en este gobierno gastamos lo que podemos partiendo de un ejercicio real de disponibilidades presupuestarias

la transparencia este compromiso se ha visto ratificado porque hemos obtenido cien puntos sobre cien en el índice de transparencia internacional dos mil catorce esto significa el cumplimiento íntegro de ochenta indicadores en áreas

las contrataciones públicas de servicios de obras y suministros o en materias de ordenación del territorio urbanismo

astiroago aterako gara baina denok batera irtengo gara esta es nuestra prioridad social no oculto los problemas y dificultades

momentos de mayor demanda de servicios públicos y sociales y de menor capacidad presupuestaria para atenderlos nos está costando mucho esfuerzo

mantener los parámetros de calidad y servicio el compromiso con los servicios sociales es compartido con diputaciones forales y ayuntamientos

y pese a todas las dificultades y limitaciones euskadi ha logrado ubicarse en los parámetros europeos conozco los problemas

en riesgo de pobreza en euskadi es del diez coma cinco por ciento y la media en el estado es del veinte coma cuatro por ciento según datos

conozco los problemas no los oculto pero la población en situación de privación material en euskadi es del cinco coma ocho por ciento para una media del nueve coma nueve por ciento en la unión europea

sin excepción nos hemos comprometido a garantizar las condiciones de vida esenciales para las personas más desfavorecidas este compromiso institucional junto a un entramado social y familiar sólido con valores es la clave de bóveda para mantener una sociedad cohesionada

aguantar la crisis ha sido el amanecer y el anochecer de este gobierno lo primero son las condiciones de vida de las personas el desarrollo humano garantizar los servicios públicos de calidad hemos puesto en marcha la receta electrónica o la nueva organización de los servicios sanitarios tanto de atención primaria como hospitalaria hemos arbitrado soluciones para los problemas de vivienda e impulsado la promoción de un parque público de viviendas de alquiler

hemos cumplido los objetivos del plan vasco de lucha contra el cambio climático y euskadi se mantiene en los puestos de cabeza del índice europeo de rendimiento ambiental

hoy contamos a pie de calle con quinientos agentes más que hace año y medio con seiscientos agentes de investigación de casos de delincuencia sobre el terreno

mantenemos las inversiones que garantizan la calidad de la educación y el avance en los proyectos estratégicos

para acercarlo más a la empresa la garantía de apoyo a la normalización del euskera o el plan heziberri dos mil veinte que simboliza un modelo educativo y pedagógico acordado y con visión de futuro me detengo en la educación la salida de la crisis más allá de medidas coyunturales

y un alto nivel de cualificación la verdadera riqueza de las sociedades reside en su saber la apelación a la sociedad del conocimiento y la innovación deben convertirse en un horizonte perseguido con tenacidad tejiendo una gran red que ponga en la misma dirección a instituciones políticas económicas y educativas a los sectores público y privado el dinamismo de la creación de riqueza surge de la innovación de conocimiento

es ahora la educación el aprendizaje y la investigación reitero que hemos garantizado unos servicios públicos de calidad reitero también que nos habría gustado hacer más

más en la dotación de infraestructuras en las que hemos debido asumir una drástica reducción en la inversión hemos debido establecer prioridades en cooperación al desarrollo tratando de mantener todos los proyectos en marcha

de todas las universidades de todas las iniciativas culturales de todos los centros de investigación responder de forma inmediata a todas las demandas

o de apoyo a la financiación de la conciliación nos habría gustado pero tenemos los pies en el suelo y no vamos a prometer más de lo que podemos les propongo una mirada a nuestro entorno somos

que mantiene las ayudas a la conciliación la única que mantiene las ayudas por hijo o hija la única que incrementa un dieciocho por ciento las ayudas de emergencia social y hemos conocido el estudio de la asociación de instituciones sociales que sitúa euskadi

gracias al mantenimiento de las políticas sociales no nos conformamos es necesario más es necesario favorecer y acompañar

de este compromiso es el programa marco por el empleo y la reactivación económica un programa que tiene su base en el acuerdo político suscrito hace un año entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

hasta dos mil dieciséis este programa marco ha propiciado un centenar de iniciativas en materia de inversión internacionalización

en vigor desde el día uno de enero también acordada con el partido popular un plan de lucha contra el fraude aprobado con las tres diputaciones forales

estos acuerdos se han sustanciado en distintos foros institucionales entre instituciones gobernadas por el partido popular por euskal herria bildu y por el partido nacionalista vasco mención expresa merece el acuerdo unánime alcanzado

estos acuerdos son un gran patrimonio para la recuperación económica acuerdos que permiten aplicar medidas para el crecimiento el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas aprobado en febrero con una dotación de seiscientos millónes los renove de rehabilitación de vivienda medio ambiente y máquina herramienta los fondos basque

dotados con veintiocho y dos coma ocho millónes de euros respectivamente el plan de internacionalización de la empresa y la estrategia basque country

el consorcio vasco de internacionalización y el programa global lehian el ris tres de especialización inteligente aprobado el nueve de abril

y aeronáutica con una inversión de catorce millónes de euros la nueva línea de financiación a la exportación para pequeñas y medianas empresas

habilitada el cinco de junio el programa de concesión de avales públicos a empresas dotado con cien millónes de euros aprobado el diecisiete de junio

ha contribuido también a superar importantes incertidumbres industriales la recuperación de la construcción naval los nuevos contratos en el sector de la automoción la evolución positiva del sector de la máquina herramienta los nuevos proyectos en energía o aeronáutica

son algunos ejemplos que certifican que la industria vasca afronta un nuevo horizonte

ha desarrollado estas medidas de forma concertada con el tejido empresarial a los hechos me remito la estrategia de fabricación avanzada nos ha permitido apoyar

el programa gauzatu de apoyo a la industria ha respaldado cincuenta y tres proyectos

el programa de ayuda a la exportación de las pequeñas y medianas empresas ha apoyado a ciento treinta y cinco empresas

el plan de innovación turística ha apoyado a mil doce empresas los planes locales y comarcales de empleo han derivado en mil ciento cuarenta y nueve actuaciones de emprendimiento

estos planes se han acordado con municipios gobernados por todos los partidos con representación municipal partido socialista de euskadi euskal herria bildu

y frutos compartidos segunda cuestión en qué situación nos encontramos estamos comenzando a dejar atrás el signo negativo

la demanda interna vuelve al signo positivo y aumentará el cero coma siete por ciento este año el consumo privado aumentará un cero coma ocho por ciento

y los servicios crecerán un uno por ciento estos indicadores estaban en negativo

y el anterior y van a evolucionar en positivo este año y el que viene de forma complementaria el sector exterior ha cambiado de tendencia y mejora

un tres coma cuatro por ciento este año cuando hace solo dos años sufrían un retroceso del tres coma tres por ciento

las empresas nos lo demuestran hemos cerrado el primer semestre con un crecimiento del cinco coma cuatro por ciento en exportaciones vamos a volver a superar

podemos aspirar a que las exportaciones representen el treinta por ciento del producto interior bruto

porque nos preocupan los riesgos e incertidumbres a los que están sujetas nuestras estimaciones si factores externos no lo impiden superaremos las previsiones aprobadas en los presupuestos el crecimiento y el producto interior bruto

el crecimiento para dos mil quince pasa del uno coma cuatro al uno coma siete por ciento estimado y el efecto

positivo sobre el empleo está aumentando la afiliación de hecho son ya cuatro meses de resultado positivo y este es el primer periodo de incremento desde que se inició la crisis en dos mil ocho no nos conformamos

que euskadi volverá a la creación de empleo neto en dos mil quince

sabemos que no es suficiente algunas grandes cifras están mejorando pero no podremos considerar la crisis como cosa del pasado mientras estas magnitudes

no comparto el pesimismo de quien no quiere ver los datos positivos y prefiere practicar una oposición

parece depender de subrayar lo negativo de nuestra situación y tampoco estoy de acuerdo con quien celebra los incipientes crecimientos macroeconómicos demostrando poca sensibilidad hacia los sacrificios y el sufrimiento de las personas reitero la necesidad de una mirada en positivo avanzamos

tercera cuestión adónde nos dirigimos y qué estamos haciendo para lograrlo la estrategia del gobierno es conocida y ha sido presentada en este parlamento hoy es posible cuantificar el balance de actuación

el programa de gobierno asume seiscientos veinticinco iniciativas para la legislatura de las que más de seiscientos se encuentran ya en ejecución y me comprometo a que las seiscientos veinticinco iniciativas se encuentren en marcha antes de finalizar el año

hemos comprometido catorce planes estratégicos para la visión de euskadimenos dos mil veinte hoy

y me comprometo a que los cinco restantes se aprueben antes de finalizar el año ciencia tecnología e innovación dos mil veinte programa marco medioambiental servicios sociales plan universitario y estrategia vasca de formación profesional el programa

seis están aprobados y doce se encuentran en tramitación reconozco que se han producido retrasos

achacables en ocasiones a nuestra responsabilidad por la búsqueda de consensos debido en otros casos a la necesidad de atender demandas de colectivos afectados en cualquier caso me comprometo a que este año el parlamento cuente con diez proyectos de ley para su debate y aprobación esta es la hoja de ruta pública y transparente del gobierno para la presente legislatura un gobierno que pisa sobre seguro que sabe a dónde va y se conduce

disciplina y acuerdo sabemos a dónde nos dirigimos

modelo propio crecimiento sostenible y desarrollo humano el pasado tres de marzo tuve la oportunidad de exponer nuestro modelo ante las autoridades europeas reunidas en el global forum el modelo vasco combina disciplina compromiso y estímulo a la economía productiva real

proponemos nuevas medidas que si el entorno es favorable nos van a permitir alcanzar resultados en tres años estos son nuestros compromisos

o proyectos de profesionales autónomos financiar setenta y cinco nuevos proyectos estratégicos de investigación

a acceder al mercado exterior contribuir a la mejora de la competitividad de mil cien pequeñas y medianas empresas ayudar

pero lo haremos de forma concertada con el tejido empresarial con la economía productiva real nos corresponde generar un clima que favorezca la asunción compartida de los malos y de los buenos momentos empresariales

y lograr la implicación responsable de trabajadoras y trabajadores en el futuro de nuestras empresas vamos a seguir trabajando para generar

nuestra masa empresarial que es la base para salir de la crisis generar empleo y aportar recursos al sistema

nos comprometemos a favorecer el crecimiento en la dimensión de la empresa vasca contribuyendo a propiciar alianzas que refuercen su competitividad en el mercado global

que hagan que todos los componentes de la misma se sientan más comprometidos con su futuro

eta motor hori geraezina da segundo las bases éticas de la acción del gobierno los estudios

coinciden en que el ochenta por ciento de la sociedad vasca se identifica con cinco premisas de contenido ético desarme y desaparición de eta sin ningún tipo de condicionamiento político memoria crítica del pasado

apoyo a todas las víctimas sin discriminaciones sin exclusiones y sin compensar la existencia de unas violaciones de derechos humanos con otras

modificación de la política penitenciaria y promoción de la resocialización de personas presas son la expresión de la voluntad de la sociedad

tercero sobre estas bases éticas adelanto las previsiones del gobierno

lo reseñable es que todos nuestros compromisos están en marcha esta es su fortaleza vamos a seguir desarrollando una por una las dieciocho iniciativas del plan

es importante lo que décimos pero tanto o más lo que hemos hecho estamos haciendo

adelanto tres nuevos hechos en primer lugar el instituto de la memoria y la convivencia en estos momentos se está debatiéndose en este parlamento

auspiciado por el gobierno es un proyecto que coincide en su filosofía con las concepciones más avanzadas en materia de política pública de memoria

que ofrecen los derechos humanos y los principios democráticos segundo el instituto incluirá la memoria histórica de la guerra civil y la dictadura

estatal paraestatal o de extrema derecha tercero el instituto permitirá abordar una política pública de memoria crítica de cada bloque de acontecimientos traumáticos en su contexto específico sin mezclar

ni compensar unos con otros sin excluir ninguno de ellos estas tres características representan lo fundamental del proyecto y tienen una importancia capital para una construcción ética de la convivencia paralelamente en este ámbito de la memoria estamos colaborando

cuyo impulso corresponde al gobierno español en segundo lugar las políticas de víctimas esta misma semana hemos presentado en el consejo vasco de participación de las víctimas del terrorismo

de víctimas esta es una cuestión fundamental para el gobierno y con la que nos sentimos personalmente comprometidos damos continuidad a los programas que se impulsan desde hace varias legislaturas y estamos renovando actuaciones

el programa adi adian de víctimas educadoras el mapa de la memoria elaborado con los ayuntamientos

esta es la iniciativa más destacada y reciente estamos hablando una por una con todas las familias de víctimas asesinadas

en materia de víctimas del terrorismo quiero también destacar el esfuerzo que estamos haciendo por reconocer y reparar a las víctimas

a pesar de todos los obstáculos no podemos comprender

a víctimas del terrorismo del gal o de organizaciones similares mantenemos firme el compromiso ético y político de verdad justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos el tercer hecho es el programa hitz eman

propositivo y plantea también iniciativas propias así reivindicamos una nueva política penitenciaria y de reintegración social demandamos la transferencia de prisiones la normalización en el acceso a beneficios penitenciarios

la continuidad de los talleres de convivencia y encuentros restaurativos el apoyo a la vía nanclares soluciones humanitarias para personas enfermas

es la vía legal un programa de apoyo a los procesos legales

un programa que necesita la contribución activa

avanzamos esta es la razón por la que el gobierno vasco

soy consciente de la trascendencia y me siento comprometido con la oportunidad para el futuro de nuestro país para legar una euskadi en paz y convivencia a las generaciones futuras seguiré poniendo todo mi empeño en que podamos conseguir

comienzo por subrayar el principio democrático en este momento toda aspiración política legítima toda aspiración nacional

en el ámbito de las democracias occidentales así hemos comprobado que en escocia ha sido posible alcanzar un acuerdo

se exprese en relación a una cuestión fundamental para su futuro desde un principio democrático y desde una postura política ha sido posible

de mil novecientos noventa y ocho este dictamen ofrece una respuesta en cuatro estadios la apertura de un diálogo político sin un resultado predeterminado la negociación de buena fe

y una clara ratificación de la sociedad ante una pregunta también clara no se cuestiona el concepto sino la forma de llevarlo a efecto

el sentimiento de identidad nacional vasca el pueblo vasco como sujeto político son una realidad incontestable

la vocación de autogobierno vasco es inveterada y se institucionaliza política y jurídicamente a través de sus derechos históricos

de forma expresa que el pueblo vasco no renuncia a sus derechos históricos es necesario

expresada de forma democrática y representada en esta misma cámara este es el fondo de la cuestión en este nuevo tiempo proponemos

la ley a la voluntad popular no apelar a la ley para evitar que esa voluntad se manifieste como está sucediendo en el caso de cataluña

sino facilitar su adecuación apelo a la altura política y a la visión de estado asumir

amparados y respetados por la constitución y los procedimientos del concierto económico son el núcleo donde mejor se contiene la realidad de auténtica soberanía compartida soberanía compartida

unilateral de los pactos alcanzados esto es la bilateralidad efectiva este es el núcleo de nuestro sistema de autogobierno que lo diferencia radicalmente de las meras descentralizaciones administrativas su actualización permite tener base competencial para además de exigir el cumplimiento inmediato del pleno desarrollo competencial

a regular ex novo nuestro papel y protagonismo en europa la participación en las instituciones europeas el desarrollo de la dimensión transfronteriza o por ejemplo el reconocimiento a la oficialidad de las selecciones deportivas vascas es necesario

el pacto en primer lugar en el seno de la sociedad vasca y en segundo lugar con el estado es un procedimiento que conecta con nuestra tradición foral sobre la que hemos construido nuestras dos experiencias estatutarias la de mil novecientos treinta y seis

nuestro autogobierno contiene una expresa reserva de los derechos históricos

a su posible actualización debemos avanzar en desarrollos más trabajados que los vigentes y en la inserción de nuevos ámbitos competenciales no previstos en mil novecientos setenta y nueve desde la necesaria confianza recíproca

y el respeto mutuo esto no significa un choque de soberanías ya que responde a la obligada adecuación del concepto de soberanía a la realidad social y política del siglo veintiuno la divergencia no radica entre autonomismo y soberanismo

fagocitadora de toda pretensión de hacer real una verdadera democracia plurinacional un concepto clave en una visión de futuro es el desarrollo de nuestro autogobierno se trata de reivindicar que nuestro desarrollo orgánico como nación como pueblo vasco en los términos del artículo primero del estatuto de gernika es un derecho

y un deber del estado y ha de suponer la base de un nuevo concierto político todo ello supondría actualizar el autogobierno avanzar en términos de mayor soberanía validar el derecho a poder ser consultados sobre nuestra vertebración política

y su interpretación están dificultando el clima para el diálogo y el acuerdo político en euskadi el primer tercio de la legislatura ha sido difícil

a crear el clima necesario para que el país avance hemos conseguido acuerdos para garantizar la actividad institucional pese a la fragmentación política

no están paralizadas por la confrontación hay presupuestos hay acuerdos hay política mi deseo es que mantengamos esta actitud por el bien del país

y la gobernabilidad del conjunto de las instituciones mi deseo es que sepamos superar los intereses partidarios en favor del interés general que no caigamos en lo peor de la política la sociedad vasca no entenderá el desgaste por el desgaste

esta es la peor expresión de la política el país necesita estabilidad y concertación el país demanda una mirada en positivo que rescate hoy la personalidad de xabier de landaburu quien poseía

de combinar un marcado sentido del realismo con un incansable activismo positivo no cabe duda de que la crisis ha acentuado nuestro realismo ahora el inicio de la recuperación debe fortalecer el activismo positivo

de la recuperación económica tenemos ante nosotros la oportunidad de mantener el acuerdo para abordar

y un consenso por el empleo juvenil hace poco más de un año en la primavera de dos mil trece mantuve dos encuentros consecutivos con los lideres de todos los partidos políticos vascos representados en esta cámara

fue individual y acudí al mismo con un documento de diagnostico de la situación económica en euskadi

convoqué el segundo encuentro este con carácter conjunto el mes de mayo presenté y compartimos en el mismo la propuesta

hoy dieciséis meses después afirmo que hemos avanzado y a los hechos me remito hoy contamos

con un horizonte hasta dos mil dieciséis un consenso presupuestario sustanciado en todas las instituciones vascas en los acuerdos de la comisión mixta del concierto económico

un consenso fiscal aprobado en las juntas generales de los tres territorios y vigente desde el día uno de enero de este año un consenso para la lucha contra el fraude aprobado por las tres diputaciones forales y el gobierno vasco el día uno de abril hemos avanzado

y esta es la senda que propongo para seguir avanzando el reto ahora es alcanzar un consenso social un consenso social de amplia base

el sistema vasco de protección social al margen de los vaivenes económicos y políticos planteo dos premisas para la sostenibilidad

y de protección social la legitimación social de un sistema de acceso universal que garantiza la dignidad a todas las personas que se encuentran en situación de dificultad y la actualización de la normativa para que sea un sistema justo y equitativo

y evitando la cronificación de la marginación como primer escalón para facilitar este consenso nuestro compromiso es proponer

la cartera el mapa y el plan estratégico de los servicios sociales que permita cumplir con el desarrollo de la ley que se aprobó en dos mil ocho

a todos los niveles políticos e institucionales con la participación de todos los partidos políticos hemos avanzado en el consenso económico presupuestario

el objetivo es avanzar ahora en el consenso social bigarren helburua oso zehatza da gazte enpleguaren aldeko kontzentzua da